buenas tardes señorías en primer lugar quiero saludar a todas las personas que nos acompañan hoy representantes y abogados asociaciones

en fin a los padres en definitiva de esta iniciativa buenas tardes a todos ellos y muchísimas gracias por venir bueno

pero espero espero y espero no confundirme también espero que sea la última por lo menos en lo que se refiere

todo parece indicar que en el próximo pleno del tribunal constitucional que tiene previsto abordar el recurso presentado por el grupo parlamentario socialista que hay que decir que fue el primero de los muchos que se presentaron que se interpusieron

de inconstitucionalidad parece como digo que en el próximo pleno

de las tasas fijas más elevadas y de todas las tasas variables

desde su instauración y con un extraordinario consenso hay que decirlo por parte no solo de los operadores jurídicos abogados procuradores notarios

asociaciones de consumidores de usuarios sindicatos en fin organizaciones sociales de todo pelo y condición lo que ha quedado claro es que estas tasas volatilizan

al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

una ley que haya suscitado tanta oposición y rechazo en todos los sectores sociales

que no fue por casualidad sino por la presión de todas esas personas que hoy están aquí y que representan a numerosos colectivos sociales y gracias también

tuvo que rectificar alguna de esas tasas previstas inicialmente pero lo cierto es que las tasas judiciales limitan derechos siguen limitando derechos vulneran derechos constitucionales de manera que sin duda

así lo habrá de recoger esa resolución del constitucional que como les decía se espera a la mayor brevedad los socialistas lo hemos venido diciendo alto y claro y repetidamente la ley de tasas judiciales no solamente es una de las leyes

sino que nacía clara y alevosamente inconstitucional

de todas las personas de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad porque consagra una justicia para ricos y otra para pobres

perfectamente y hay que reconocer que y hay que darle al cesar lo que es del cesar y a dios lo que es de dios que consiguió su propósito que era limitar el acceso a la justicia y disuadir a la ciudadanía para no acudir a los tribunales porque a nuestro juicio está claro yo creo que medianamente claro y creo que nadie duda en ello que se produce

disuasorio casi absoluto cuando por ejemplo se reclaman contra sanciones de carácter administrativo multas de pequeña entidad

el coste de la propia sanción y ello no solamente limita el acceso de los ciudadanos a la justicia sino que tiene otro efecto también y es que no se garantiza como se debiera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y ocurre lo mismo también en la vía del recurso

superan de manera importante el salario mínimo interprofesional lo que en definitiva supone dedicar a la tasa un porcentaje muy importante de la renta

es que es una ley que afecta de manera irremediable la posibilidad de reclamar y exigir justicia

hemos pasado de la tutela judicial efectiva a la tutela judicial

como ya he comentado y como ya saben ustedes hace ahora un año debido sobre todo a la presión de los operadores jurídicos instituciones etcétera el gobierno del señor rajoy aprobó en el real decreto ley uno barra dos mil quince la exención

físicas pero ha fecha de hoy se siguen manteniendo las tasas judiciales para algunas entidades sin fines lucrativos como ong organizaciones no

lo que hacen es defender intereses públicos y también se siguen manteniendo

y autónomos esas entidades recogidas en la ley como de reducida dimensión que pagan el impuesto de sociedades mayoritariamente son pequeñas empresas

que tienen una figura societaria por ejemplo de una sociedad limitada y muchos autónomos y son los sujetos más afectados negativamente por esas tasas y más en una situación como la actual de crisis económica ya que se ven imposibilitados a acudir a la justicia simplemente por no poder asumir la carga de pagarlas

habituales como remozar o pintar una vivienda o sustituir la grifería o

para poder reclamar una deuda que les ha producido en su economía personal de sus sociedades de su trabajo un agujero terrible deben pagar tasas sin saber cuándo se va a ver el asunto si van a ganar o no van a ganar el procedimiento

esa sentencia y cobrar en definitiva lo efectivamente adeudado

y si ese impago lo efectúa una administración apaga y vámonos porque la jurisdicción contencioso administrativa señorías prevé tasas superiores a las de la jurisdicción civil y eso aparte de que la condena en costas para las administraciones públicas aunque prevista

al sol yo creo señorías que es pacífica la consideración de que la administración de justicia es un servicio que necesita mejoras y reformas en profundidad como el comer necesita mejorar y facilitar el acceso

necesitan mejorar y reducir sustancialmente los tiempos de resolución mejorar sustancialmente los medios personales y materiales mejorar su estructura pero la ley no ha cumplido ni uno solo de esos supuestos

loables objetivos no ha mejorado el servicio no ha contribuido a sostener ni mejorar de la actividad judicial no ha contribuido de ninguna manera es más el ministerio no sabe dónde está el dinero de las tasas judiciales y por lo tanto no ha contribuido a sufragar la justicia gratuita que era uno de sus objetivos no se han reducido ni un solo de los atrasos es más los juzgados están

con tiempos mucho mayores que los que estaban anteriormente en definitiva solo hay una cosa clara indudable y es que las tasas judiciales limitan derechos limitan nuestros derechos

esta iniciativa lo único que pretende es recuperarlos hoy damos un paso pequeño pero firme en ese empeño

todas las veces que haga falta y por eso presentamos esta iniciativa a iniciativa de todos estos grupos que están representados hoy ahí

una enmienda transaccional que yo creo que es impepinable que todo el mundo la apoye fundamentalmente porque entre otras cosas dentro de nada como digo va a haber una resolución del tribunal constitucional en ese sentido

digo en muy poco plazo de tiempo yo agradezco a los grupos que han transaccionado con el grupo socialista tanto el grupo nacionalistas vascos como el grupo de eh bildu la

para el acuerdo y solicito del resto de los grupos un apoyo que va de suyo que debiera ser favorable al contenido
de la enmienda de transacción nada más y muchas gracias eskerrik asko gallastegui

el grupo socialista habla en su justificación de la justicia como pilar básico del sistema

de nuestra constitución señala la justificación de su iniciativa que la justicia tiene que ser ejercida por un poder judicial independiente

un sistema de justicia gratuita eficiente para las personas necesitadas

y ciertamente nos interesa mucho su apelación a la justicia independiente dado que hoy la justicia en españa no es independiente politizada está colonizada por los principales partidos políticos españoles solemos decirlo esto en numerosas ocasiones y hoy también es buen momento para recordarlo la justicia en españa esta colonizada por los partidos políticos y está colonizada también por el partido socialista obrero español

está colonizado el tribunal supremo está colonizado y el tribunal constitucional está colonizado y además no se han dado pasos para la supresión de los aforamientos en este punto animo al grupo socialista al partido socialista obrero español al señor pedro sánchez

ares a que en sus negociaciones inminentes con el resto de partidos políticos para facilitar la investidura del señor pedro sánchez y formar un gobierno nuevo en españa incluyan

indispensable para también regenerar la política en españa la necesidad de descolonizar la justicia de los partidos

de regeneración de la democracia y el señor pedro sánchez y también el señor ares creo que tienen abierta esa posibilidad que se verá plasmada o no en los próximos días y en las próximas semanas la señora gallastegui realiza una detallada cronología política de los hechos que nos traen al debate de hoy la ley efectivamente del dos mil doce reimplanta en españa las tasas judiciales con un carácter general

de las tasas judiciales la ley de dos mil doce de veinte de noviembre es la que

parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional

se han interpuesto numerosos recursos de inconstitucionalidad se han planteado numerosas cuestiones de inconstitucionalidad se han instado recursos de amparo de justiciables indefensos y la defensora del pueblo recomendó en su momento su modificación acertadamente su justificación por lo tanto también recuerda que por el real decreto ley dos mil trece de veintidós de febrero se modifica levemente la ley rebajando la cuota variable pero

por su importe no impiden el acceso a la jurisdicción por motivos económicos y ese ha sido el efecto que ha producido al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas la capacidad

por el defensor del pueblo andaluz en relación a la ley

que esta ley no ha solucionado el problema de los retrasos en la justicia vasca y ha privado del acceso a la justicia a quien no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas recuerda a las insuficientes modificaciones habilitadas por el real decreto ley uno barra dos mil quince de veintisiete de febrero para proponer finalmente la derogación de las tasas judiciales establecidas en esa ley ya que vulneran la tutela judicial efectiva e impide la defensa

y disuasorio sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto imposibles de pagar para las entidades sin fines lucrativos y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión por lo tanto estamos de acuerdo con lo que se plantea en esa justificación y con la propuesta ya sabíamos que la justicia pilar del sistema democrático no es igual para todos en españa

la politización de la justicia los aforamientos

botín en el momento en que fue aplicada o también las tasas judiciales en su momento upyd presentó en el congreso de los diputados una enmienda de totalidad

nuevas barreras al acceso a la justicia aunque se hubiera alegado la pretensión

situación de saturación de los juzgados compartimos por tanto las ideas recogidas por el grupo

y también las ideas recogidas en la transaccional que se ha firmado pero ciertamente teníamos dudas en relación al punto dos de la iniciativa original punto dos de la enmienda transaccional en la enmienda de totalidad presentada por upyd en el congreso

once considerando que su aplicación supone infringir abiertamente la ley de tasas y precios públicos que establece que las mismas deben servir exclusivamente para cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya el hecho

puedan vincularse a otro servicio distinto en este caso a la justicia gratuita de ahí nuestras dudas en relación a la iniciativa original

que planteaba la supresión de ese punto número dos en todo caso nuestra prioridad recogida en nuestra enmienda es restaurar la justicia

tanto por su despolitización como por garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos por lo tanto podemos concluir que compartimos en general

transaccional y por lo tanto tendrá nuestro voto favorable gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildutik arzuaga jauna zurea da hitza

batzuetarako aquellas tasas que se preveían en la ley diez barra dos mil doce han ido reculando han tenido un recorrido menguante

quiero pensar que por la presión de operadores jurídicos de profesionales de usuarios y también espero por posicionamientos como los que hoy vamos a aprobar aquí

modificó el régimen rebajando la cuota variable posteriormente

introducía ciertas exenciones al pago de tasas

a las personas físicas un paso que consideramos importante hoy siguiendo ese proceso lógico solicitamos el siguiente paso

y medianas empresas y también a las organizaciones no gubernamentales consideramos que son las personas jurídicas las más golpeadas por la crisis las más

que no tienen ánimo de lucro y trabajan por los intereses públicos quienes debemos rescatar de este injusto la lógica es sencilla inditex y cualquier tienda local no pueden pagar lo mismo por acceder a la justicia no pueden tener el mismo tratamiento iberdrola que un taller de electricidad petronor

se plantean en esta pnl dos cuestiones básicamente en primer lugar

a las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones no gubernamentales y en segundo lugar lo relativo a la aplicación de la recaudación por las tasas recaudadas

como suele decir usted claro como el agua clara desde la primera respuesta escrita

en reiteradas preguntas de la señora gallastegui y también de forma verbal en esta misma cámara a raíz de interpelación también de la señora gallastegui sustanciada con fecha

enmienda de totalidad al proyecto de ley y posteriormente

que fue sustanciada en debate el once de marzo del dos mil catorce y también en esta cámara en el segundo pleno de esta legislatura el treinta y uno de enero del dos mil trece a raíz de una pnl también del grupo socialista en el sentido de excluir

también podíamos haber planteado en la exención de la pymes y de las organizaciones no gubernamentales también hemos manifestando al igual de otros grupos del parlamentario

aunque entendemos que se debe garantizar que nadie vea limitado

en este sentido nuestra postura es abalada por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos que dicen que un sistema de tasas no es per se contrario al derecho de acceso a la justicia

alegia gaitasun ekonomikoa kasuan kasu baloratu behar dela y serán constitucionales siempre y cuando por su cuantía no limiten o impidan el acceso de la personas a la tutela judicial efectiva respecto a la evolución legislativa de las tasas judiciales tras las aprobación

de tasas judiciales que derogó el sistema de tasas judiciales ha habido algunas modificaciones legislativas pero que sustancialmente no han afectado al derecho a la tutela judicial efectiva hasta que llego la ley diez barra dos mil doce de veinte de noviembre de tasas judiciales

y se tramitó por urgencia aprobándose en el senado el catorce de noviembre a pesar de contar con enmiendas de totalidad de todos los grupos parlamentarios a excepción lógicamente del partido popular

a la totalidad de todos los grupos parlamentarios siete en concreto todos los operadores jurídicos abogados procuradores jueces fiscales secretarios judiciales funcionarios incluso el propio consejo general del poder judicial asociaciones de consumidores sindicatos y plataformas ciudadanas

hicieron oídos sordos y aprobaron la ley de tasas en absoluta soledad además en sentido literal porque el resto de diputados y diputadas de los otros grupos abandonaron el hemiciclo

fueron incapaces de abrir ningún proceso de diálogo el señor rajoy y su gobierno

y más diálogo para la búsqueda de acuerdos diálogo que ahora curiosamente sí reclaman de aquellos lodos estos barros después

el real decreto ley tres barra dos mil trece y el real decreto ley uno barra dos mil quince

compartimos lo planteado por eh bildu en la enmienda de totalidad que curiosamente pues también iba en el hilo argumental de la propuesta inicial del grupo socialista aunque luego en la parte dispositiva no se refería específicamente a la exención de las pymes y de las organizaciones no gubernamentales y lo planteamos respecto a las empresas grandes en la línea de lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley cincuenta y tres barra dos mil dos

a ocho millónes de euros y no las pymes ni pequeñas empresas

esto es lo que se dice o lo que se ha argumentado también la justicia de ricos para pagar a los que

económicos respecto a la segunda cuestión la aplicación de lo recaudado a las tasas judiciales fruto de la citada ley hemos de decir que la actitud durante estos más de tres años del gobierno español en esta materia se puede calificar de vergonzosa una autentica tomadura de pelo

haciendo y deshaciendo de forma unilateral y cambiando de criterio unilateralmente en cada reunión el gobierno español que inicialmente defendió el nuevo régimen de tasas argumentando que la recaudación resultante de las mismas

establecida en el artículo once y de ahí tres años después nada se ha hecho hasta este momento no existe esa vinculación y desconocemos hacia donde han ido los ingresos que al mismo tiempo

paralelamente al aprobar el real decreto ley tres barra dos mil trece amplió el ámbito subjetivo de los beneficiarios de la justicia gratuita y elevó los umbrales de su cuantía que podemos compartir ese criterio

que tenían transferencia en esta materia como es el caso no voy a hacer repaso de los diferentes criterios

y dejando al margen los compromisos y las palabras dadas en todo este proceso el único dato objetivo es que los quinientos sesenta y cuatro millónes recaudados

por la aplicación de las tasas judiciales últimos datos oficiales conocidos a día de hoy cuatro de febrero de dos mil dieciséis tras más de tres años de vigencia ni un solo euro de lo recaudado a través de las tasas judiciales

las comunidades autónomas con competencia como esta lo están haciendo

del ministerio de justicia decía el señor gallardón en una respuesta a una pregunta del señor olabarria que se iban hasta un límite razonable lo que vaya a costar de más a las comunidades autónomas

se lo puedo asegurar hasta ese límite de tres veces la desviación del ministerio tendrá cargo por ampliar los beneficios de la justicia gratuita también hemos observado con el planteamiento inicial de la propuesta del grupo socialista observamos una rectificación implícita del planteamiento mantenido por la señora gallastegui con anterioridad en esta cámara

de siete de junio de dos mil trece criticaba duramente la posición del gobierno vasco en cuanto que según usted intentaba beneficiarse de una ley que no apoyaba parece que ahora con su planteamiento inicial

planteadas a lo largo del dos mil catorce pasa a ser bastante incisiva en el planteamiento de la reclamación de la parte que corresponde para la financiación de la justicia gratuita ahora en cambio

pues sí nos gustaría que lo rectificase expresamente porque fue bastante dura con el consejero en esta materia por tanto la cuestión de esta segunda cuestión estamos ante una tasa estamos ante una tasa y como bien ha explicado el señor olabarria en el congreso en el debate de veintidós de octubre de dos mil doce

no es posible vincularlo a otro servicio y por eso en la

para que en el marco de las relaciones económico financieras existentes entre la comunidad autónoma

articulen mecanismos para compensar el sistema de asistencia jurídica gratuita a través de los ingresos derivados de las tasas y depósitos judiciales hemos incluido también no solo lo recaudado por las tasas

ya que la ley orgánica uno barra dos mil nueve en la exposición de motivos decía que aparte de la modernización de la justicia también esos recursos esos ingresos se iban a destinar a financiar el beneficio de la justicia gratuita agradecer la predisposición a llegar a un acuerdo de la proponente y de bildu y solicitar el apoyo del resto de la cámara a la enmienda transaccional acordada besterik gabe

la verdad es que no se puede decir que la ley diez barra dos mil doce fuera una ley exitosa

y los fines que decía perseguir no parece que se han conseguido

a la justicia gratuita ahora bien una cosa es eso

porque señora gallastegui su discurso de hoy para el dos mil doce a lo mejor valía

es que dice las tasas judiciales vulneran derechos oiga ocho años de gobierno socialista

sin suprimirlas e incrementándolas e inventando nuevas y para personas físicas

o no puede haber tasas judiciales y ahora me vengo a la transaccional que ustedes han firmado y ustedes no dicen que se quiten las tasas judiciales

a las pequeñas y medianas empresas y a las organizaciones no gubernamentales y yo me pregunto y una organización no gubernamental qué es la fundación bbv por poner un ejemplo o la del banco santander

de qué estamos hablando y las pymes son pobres

con problemas y no conocemos pymes ricas cuál es el planteamiento de los grupos en esta cámara están ustedes a favor de quitar todas las tasas vulnera derechos habrá que quitárselas a todo el mundo desde luego nosotros somos partidarios

del partido nacionalista vasco que nos acaba de hacer aquí y nos acaba de decir como decía

punto uno de su enmienda transaccional que se mantengan las tasas

no que se supriman las tasas y punto dos que esas tasas vengan al gobierno vasco

se pueden cobrar tasas es un derecho se vulnera la ley un poquito de coherencia se puede pedir aquí

digo yo desde cuando una empresa que factura ocho millónes de euros que a lo mejor está en quiebra aunque facture ocho millónes de euros es una empresa rica

o facturaba va a tener algún juicio

rica y una pobre qué tiene que ver la diferencia de pymes y grandes empresas en ese aspecto cuando hablamos de asociaciones

pero qué pleitos tiene que tener una ong en españa contra quién por qué

la señora gallastegui me dice no los recursos de las multas de tráfico qué

sabe usted que las personas físicas están exentas de las tasas sí lo sabe porque me saca

es uno de los argumentos para defender su propuesta hoy me dice muchos autónomos como no están los autónomos son personas físicas

de momento son personas físicas por lo tanto están exentos de las tasas

en esta cámara hay que cobrar tasas judiciales

o no se pueden cobrar porque vulneran derechos porque la enmienda que ha firmado bildu

y partido nacionalista vasco no dice que se derogue la ley diez

y que se declare también exenta como ya están las personas físicas a las pequeñas y medianas empresas

cuando los tres grupos que han firmado esto dicen que se mantengan las tasas y punto dos

indica judiciales en los juzgados en garantía de lo que sea

los depósitos judiciales entonces ya no son judiciales son administrativos qué tienen que ver los depósitos judiciales con los supuestos ingresos de tasas nada nada entonces qué están planteando aquí

punto tres el parlamento vasco insta al gobierno vasco y demás instituciones públicas a aproximarse a la media presupuestaria europea para la financiación de la justicia bueno por lo menos aquí ha mejorado la propuesta del partido socialista porque decía que era el gobierno de españa y parece que nos habíamos olvidado que las comunidades autónomas tienen competencias sobre esta materia

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en el ámbito de sus competencias garantice el derecho a la tutela efectiva de la ciudadanía vasca parece ser que no lo hace suficientemente y le tenemos que instar a que lo haga nosotros no tenemos ningún problema

que lo hacía moderadamente bien pero bueno no tenemos ningún problema en instarle a usted

se siga prestando el derecho y se garantice el derecho a la tutela efectiva

sus obligaciones nosotros no vamos a ser más papistas que el papa

necesitan hacerle este requerimiento

al gobierno vasco y a mí sí me gustaría si de verdad algunos vienen y dejan de hacer demagogia

las tasas vulneran derechos sí o no porque si vulneran las quitamos todas yo soy partidario

ustedes creo que no en cualquier caso como ya les he dicho desde el minuto uno es una ley que en fin la calificación más suave es de llamarla ave fallida porque si en tres años de recorrido ha tenido tres modificaciones y se suponía que iba a servir para financiar mejor

bien por partes primero para aclarar desde nuestro punto de vista una cuestión que parece que ha suscitado dudas en todos los grupos

al asunto de la vinculación de la tasa con el servicio público al que se quiere

y yo creo que en este caso no tiene porqué haber ningún problema entre otras cosas porque hay que hacer una lectura

y entender que el servicio público de justicia el sistema de justicia

de asistencia jurídica gratuita eso para empezar yo creo que por lo tanto no tendríamos ningún problema con esto pero en cualquier caso yo creo que la redacción que se ha dado al punto

abierto o cerrada la posibilidad de que haya cualquier asunto de carácter de recurso ante cualquier tipo de tribunal

me decía el señor zorrilla que ha habido un cambio

la apreciación por parte del grupo socialista y concretamente de esta parlamentaria

planteamiento que se dice en aquella interpelación al consejero en relación con las tasas y la posición que ahora tenemos que

percibido por la recaudación de ellas venga a las comunidades autónomas conforme dice la ley

bueno la situación es radicalmente diferente si todos los que estamos aquí damos una mirada atrás

era una posición clara porque la viceconsejera de justicia

la justicia es cara y hay que pagarla nosotros estamos en contra

y eso no es exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora es decir una vez que el parlamento

claramente en contra de la aplicación de las tasas judiciales

no solamente no voy a recurrir no voy a actuar no voy a activar los medios

en estos momentos en el apartado cuatro de la enmienda transaccional sino que además quiero el trocito que me pueda corresponder ni uno

el señor damborenea que a ver qué pasa con las tasas bueno aquí

meridianamente clara es que la ley esta ley de la que estamos hablando hoy la ley diez barra dos mil doce de veintiséis de noviembre

años no estoy hablando del gobierno de zapatero por lo tanto ni de ningún gobierno socialista

todas la única ley que instaura reinstaura con carácter general las tasas judiciales es ley que hicieron ustedes con el posicionamiento en contra de todo lo que se mueve en el mundo porque nadie

nadie concitó con ustedes el más mínimo acuerdo y ustedes establecieron unas tasas

a las que les asignaron una cuantía tan sumamente elevada que además de tener un carácter meramente de hacer cajita de hacer caja de recaudar

frontalmente como dice la proposición en su parte expositiva con derechos de protección constitucional es decir esta ley vulnera derechos

y por eso ustedes han tenido que hacer efectivamente eso que usted le parece tan divertido que es ir modificando en este plazo de tres años sucesivamente esta ley

y reconocer el error es de sabios y entonces lo que corresponde reconocerlo y además en definitiva aprobar con el resto de las fuerzas políticas de este parlamento esta enmienda transaccional

salir pero sí tal vez para leer una pequeña intervención una parte de la intervención que ya en aquel debate

decía el señor damborenea no deja de ser peculiar decir que todas las personas físicas deben de quedar fuera se supone que del cobro de las tasas

en el congreso de los diputados y a lo mejor el panadero que tiene una sociedad en la panadería que es con la que lo lleva ese sí tiene que pagar las tasas

su proporcionalidad se preguntaba usted bien es esta la cuestión de proporcionalidad porque a mí me da la impresión que en cierta manera usted lo que está haciendo es

de la línea de defensa primero dijo que estas tasas se tenían que aplicar a las personas físicas después se dan cuenta de que no es justo entonces se introduce una reforma hoy defiende que se mantenga

ong ya que no va a votar o no va a aprobar o no va a apoyar con su voto la transacción que hoy traemos y lo que me pregunto es si mañana

tribunal constitucional también se va a expresar sobre esta cuestión entonces

me pregunto si usted entonces defenderá que se mantenga la tasa para las grandes empresas y creo que aquí está y creo que por eso adelanta usted que no y por eso creo que usted dice que bueno que realmente esta ley fue una ley fallida que fue una ley que no tiene sentido

sido sancionada yo creo que es una progresión lógica lo que hoy estamos planteando primero personas físicas después

y entremos entonces en el debate de la proporcionalidad porque entonces nosotros diremos que estas tasas sí que consideramos que se tienen que mantener a las grandes empresas

eskerrik asko señor damborenea creo que este parlamentario ha sido bastante claro en algunas de las cuestiones que ha planteado primera tasas sí o tasas no

siempre que no limite la capacidad para acceder al derecho de la tutela judicial efectiva más claro el agua para quién para quién pues también lo hemos dicho para quién pues tal y como decía la ley el artículo treinta y cinco de la ley cincuenta y tres barra dos mil dos para los que tienen obligación las empresas cuyo importe neto de cifra de negocio fuera superior a ocho millónes de euros siempre también

que esta limitación esta tasa no limite el acceso a la tutela judicial efectiva de estas personas jurídicas

y sí para las grandes empresas esa tasa tiene que ser para el que presta servicio

quién presta el servicio la discusión puede ser si el servicio lo hacen los jueces y secretarios judiciales o aquí como nosotros tenemos

pues que esa tasa judicial si el servicio lo presta el estado o lo presta la comunidad autónoma ese servicio de justicia

reclamamos esa tasa por eso décimos que hay que establecer mecanismos que permitan en su caso el ingreso de esta tasa por la prestación del servicio en la administración que asume el mayor coste de ese servicio

orgánica uno barra dos mil nueve de tres de noviembre que dice dice

implantación se vincula directamente al proceso de modernización de la justicia

y a financiar el beneficio de justicia gratuita lo que pasa es que tampoco se estaba cumpliendo

hemos acordado el incluir lo que sean las tasas judiciales y los depósitos judiciales en caso de que no se devuelva lógicamente si se devuelven no se van a poder

lógicamente corresponderán en este caso se quieren vincular o compensar con la justicia gratuita hablaba usted de coherencia hay que yo le diría que hay que reconocerle valor señor damborenea para hablar de coherencia y entiendo también que tiene un autentico papelón porque lo escrito se lee

una parte del pleno del treinta y uno de enero del dos mil trece que yo también la tenía subrayada pero también dijo otras cosas usted dijo

el señor gallardón en su momento que he leído la reforma damborenea dijo

del señor mariano rajoy es para financiar la justicia gratuita la justicia gratuita que pagan las comunidades autónomas y evidentemente la comunidad autónoma que quiere recibir esos ingresos

podrá hacerlo punto dijo y en otro párrafo dice el gobierno del partido popular ha dicho que eso es para financiar la justicia gratuita que pagan las comunidades autónomas por lo tanto

cuando corresponde hacerlo ese es el afán recaudatorio del gobierno central cero euros cero euros eso decía el treinta y uno yo y que conste señor damborenea que estoy plenamente convencido de que cuando dijo esto lo pensaba en aquel momento pero el tiempo es un factor inexorable que da y quita razones y a usted se la ha quitado de forma concluyente porque no es que la administración

comunidades autónomas cero cero no sé si es coherencia o no es coherencia como decía no voy a hacer referencia

desde esa afectación inicial del anteproyecto pues haciendo un balance de las comisiones sectoriales y de reuniones me iría simplemente al final que es una pregunta de un parlamentario catalán señor jané guasch con fecha veintidós de abril de dos mil quince que el señor ministro dice sin ningún rubor a pesar de todo lo que hemos leído

con la financiación de la justicia gratuita que son cuestiones totalmente distintas hay que echarle valor como decía antes hay que echarle valor y coherencia por lo tanto

a lo manifestado por el grupo socialista dice que queríamos una posición clara del gobierno vasco pues yo creo que la posición del gobierno vasco fue clarísima desde el primer momento como le he dicho antes y en este sentido

haciendo los últimos segundos de la intervención el escenario es otro actualmente

y lo que instamos a que si esa voluntad del partido socialista de euskadi tiene influencia y se refleja en el partido socialista obrero español junto con el apoyo del resto de grupos parlamentarios que parece que están en esa línea pues trabaje en modificar la ley y

señora gallastegui esta es la única ley la del dos mil doce que instauró las tasas judiciales no es cierto y lo sabe si además no hace falta decir lo que no es cierto

existen las tasas judiciales que ustedes las incrementaron con el proceso monitorio para que las pagaran las personas físicas y además hicieron otra cosa que a lo mejor es peor que impusieron el devengo de costas en el contencioso administrativo en contra de los ciudadanos que recurrían el contencioso si perdían obligatoriamente tenían que pagar las costas de la administración cosa que hasta ese momento

y eso lo hicieron ustedes vamos a ver yo no sé si algunos me han entendido no yo no digo que sea una cuestión de proporcionalidad el pagar las tasas no y yo cuando le puse ese ejemplo se lo puse porque quién es más rico quién es más rico

de derecho oiga poner una tasa vulnera el derecho de acceso o no

cómo se pone esa es la primera pregunta porque en la primera intervención de todos ustedes se vulneraban todos los oiga poner tasas se vulnera derechos usted dice no yo quiero poner tasas usted dice no

y yo que venía dispuesto a votar el primer punto de la propuesta del partido socialista para derogar esta ley me encuentro con que los tres grupos no quieren derogarla por qué

la cuarta modificación de la ley dos mil doce si todavía va a ser una ley esta con mucho recorrido

y ahora ustedes están pidiendo la cuarta porque ya no piden ninguno la derogación de esta ley

y cuando usted me dice soy contradictorio no yo le he dicho yo dije por qué me parecía bien

yo dije que me parecía bien que yo entiendo como ustedes mismos han dicho que está declarado en europa que poner tasas no vulnera el acceso verdad

si el partido popular hace una ley si lo hacen los demás no no se vulneran es fantástica

es fantástica la ley pero a pagar y todavía

eso a mí me parecía bien esa ley la finalidad de ese ingreso financiar mejor la justicia gratuita y yo se lo he dicho en mi primera intervención ha fallado en eso

a votar la derogación de esta ley pero no me dejan porque todos ustedes quieren que se mantenga la ley y que se haga una cuarta modificación

aquí hay mucho personaje que viene aquí a decir que se vulneran los derechos pero luego todos quieren hacer caja a costa de qué

de los ciudadanos porque claro la cifra de negocios

ustedes supongo que con esto pretenden por su discurso es la que pretenden volver a poner

grava a los más ricos o a los no más ricos desde bildu se nos dice nosotros estamos dispuestos a que sigan pagando tasas las grandes empresas

debiera usted saber que hay autónomos muy ricos y debiera usted saber que hay

qué pasa si es gran si uno es alto tiene que pagar más que si es bajo qué tendrá que ver el tamaño

qué tendrá que ver la facturación con los ingresos con quién gana más y ustedes también lo fijan

a la facturación y no al beneficio y si se quiere una proporcionalidad evidentemente habrá que ver el beneficio no la facturación

y eso sirve solo para empresas o sirve también para personas físicas que eso era lo que yo le decía a usted en el anterior debate a usted no y a todos ustedes sirve para empresas y

solo o no sirve también para personas físicas yo en cualquier caso les diré

a que garantice el derecho que por lo visto no lo hace a la tutela efectiva lo haremos

ahora nos hemos quedado gracias a la transacción sin la posibilidad de votar la derogación de esa ley

muchas gracias señora presidenta señorías el proceso de matriculación de los centros públicos y concertados tanto en educación infantil como en primaria y en secundaria

tiene establecido un calendario común de presentación de solicitudes para la admisión de los alumnos y las alumnas dichas solicitudes también pueden ser complementadas online mediante una aplicación informática facilitada por el departamento de educación a la que se deben adjuntar escaneados los documentos

en ese sentido las personas solicitantes autorizan a la dirección de centros escolares a comprobar en otros organismos públicos en otras administraciones la veracidad de los documentos presentados sin embargo los ciudadanos tenemos derecho a no presentar ante la administración aquella documentación

en su poder o que no es necesaria para el procedimiento del que se trate esto ya se contempla en un artículo es decir la normativa es extensa

de diferentes leyes no quiero enumerarlas pero en todo caso sí que queremos aquí hacer hincapié en que efectivamente las sociedades avanzan los cambios que se van produciendo se producen cada vez con mayor rapidez

las administraciones creemos que deben adaptarse a esas nuevas realidades a las nuevas necesidades de la ciudadanía una ciudadanía que por otra parte

plenamente preparada para ello y además es consciente de sus derechos de sus capacidades que están acostumbrados además

por lo que el gobierno de españa impulsó el pasado octubre de dos mil quince la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas una ley que entre otras cosas trata de avanzar

las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos adaptándose a las nuevas realidades de nuestro tiempo y evitando duplicidades

poder ofrecer un servicio más eficaz al conjunto de la ciudadanía han sido muchas como les decía las leyes que se han ocupado de esto la

la ley cincuenta y ocho barra dos mil tres ley general tributaria la once barra dos mil siete de acceso electrónico esta ya dio carta de naturaleza legal al establecer el derecho a los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas

de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse a nuestro juicio la administración vasca puede

una forma excepcional especial de gestión en los procedimientos sino que debe constituir una actuación habitual de las administraciones porque una administración que apuesta por el funcionamiento electrónico no solo sirve mejor a los principios de eficiencia y de eficacia

ahorra costes a la ciudadanía a las empresas

de los interesados la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita a nuestro juicio el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

información puntual ágil y actualiza esa información de los propios interesados y nuestra legislación no es una excepción el decreto

de administración electrónica así como el convenio de colaboración entre el gobierno vasco y las diputaciones ya permitía

encargar de que esto funcione de una manera definitiva la finalidad principal de estos acuerdos y de este decreto efectivamente era facilitar el ejercicio de ese derecho

administraciones tenemos que facilitar todo ese procedimiento todos esos procesos

patente por toda esta legislación también por los pasos dados en nuestra comunidad tanto ciudadanos como empresas tienen ese derecho que especialmente cuando se trata de documentación que no es necesaria para el procedimiento de que se trata no tiene porqué exigirse su presentación

como decía esa regulación suficiente regulación al respecto sin embargo creo por eso hemos traído esta iniciativa hoy aquí que muchas administraciones empresas instituciones en el sector público desconocen la existencia de este derecho básica

de situaciones que incomodan que exasperan a los ciudadanos en su relación con las administraciones hemos traído el ejemplo

al proceso de matriculación en centros educativos de la capv podríamos haber puesto otros ejemplos pero efectivamente cuando se va a solicitar la admisión esta se puede realizar por dos canales uno es el presencial tiene que ir

del alumno o de la alumna al centro que eligen como primera opción tienen que presentar toda la documentación in situ

como antes les detallaba en ambos casos se deben entregar una serie de documentos ya salvamos el de la renta pero se tienen que presentar fotocopias del libro de familia correspondientes al alumno fotocopias

dni de ambos certificación del empadronamiento

del cumplimiento del protocolo establecido por el departamento de educación en el caso de familias separadas o divorciadas

del padre de la madre de los miembros de la unidad familiar fotocopias de la cartilla de la familia numerosa documentos acreditativos

por supuesto muchos de estos datos los conoce ya la administración documento

y de documentos que efectivamente muchos de ellos obran en poder de la administración de la misma forma que no se entrega la renta anual de la unidad familiar ya que basta con autorizar al gobierno vasco

por parte del departamento en la correspondiente hacienda foral no se puede entender sin embargo que el propio departamento solicite

está en el centro es decir esa información la tiene el departamento debe disponer de ella el departamento o algo tan sencillo como el certificado de empadronamiento

que acrediten la paternidad todo ese tipo de información que obra ya en poder de

varias fotocopias del libro de familia etcétera cuando existe ya un registro civil que precisamente

facilitar agilizar los trámites burocráticos eliminar trámites innecesarios y configurar un registro que debía ser ya electrónico

rápido accesible y único por todo ello y no me extiendo más por todo ello presentamos hoy aquí esta iniciativa que persigue la mejora de la gestión en los procedimientos de la administración que creemos que puede avanzar

ahorrando costes esfuerzos especialmente esfuerzos a la ciudadanía a ciudadanos a empresas y que facilita desde luego el ejercicio de ese derecho que hemos venido poniendo de manifiesto desde el inicio de mi intervención ese derecho a no aportar los datos y los documentos que obran en poder de las administraciones públicas cuando realicen

a todos los grupos la disposición que desde el primer momento han tenido para apoyar esa iniciativa para alcanzar un acuerdo

el grupo nacionalistas vascos y el grupo popular y desde luego esperar que se tomen las medidas adecuadas lo más urgente posible

efectivamente otra vez estos trámites a las familias el próximo año cuando llegue el momento en el que nos encontramos que es un momento de prematrícula en
infantil primaria y secundaria en los centros públicos y concertados de la cav nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

este mediodía la presidenta ha leído dos declaraciones institucional y su firma está mire

la de acería compacta de bizkaia estamos juntitos aquí

y el partido popular firmado la segunda declaración

un poquito más separados pero también entonces no sé cuál es el proceder y no sé cuál es el criterio que tiene el partido popular precisamente para que en una cuestión que estábamos de acuerdo no nos haya dejado firmar porque ha sido así usted lo sabe

nosotros no vamos a caer en su intolerancia no vamos a caer en sus paranoias porque lo importante son las familias y los niños y las niñas para euskal herria bildu

señorías fue oportuna la propuesta presentada por el grupo popular estuvo bien

la transacción a la que hemos llegado hemos incorporado algunos elementos y yo creo que debemos felicitarnos porque

en un momento en el que están en plena matriculación y como ya se ha dicho aquí tienen que reunir documentación de diversas administraciones publicas

nosotros pusimos en marcha en algún tiempo la matriculación y efectivamente tuvimos que enfrentar algunos problemas incluso con alguna de nuestras haciendas forales

esto parece que se ha avanzado aquí pero

que la administración educativa suscriba convenios con aquellas administraciones con las que todavía no tenemos aportaciones

y es preciso que lo hagan es decir pasar del papel a la práctica es muy importante también es muy importante el otro elemento que se ha incorporado

efectivamente esas administraciones sepan que lo que están suscribiendo se corresponde con la realidad y esto también

presentada por el grupo popular más oportuna es la enmienda de transacción a la que hemos llegado así que yo creo que felicitarnos para todos por todos y a ver si podemos conseguir que el nombre de todos

entre unas instancias y otras a día de hoy hay suscritos varios convenios con algunos ayuntamientos grandes y medianos que disponen de recursos informáticos como son el de vitoria gasteiz el de donostia bilbo barakaldo ermua txorierriko mankomunitatea

también desde el pasado mes de noviembre hay suscrito un convenio con las diputaciones forales convenio que ya anunció en su día

josu erkoreka ante este mismo pleno se trata de un convenio de colaboración entre la administración pública de la comunidad autónoma de euskadi

para el intercambio de información por medios electrónicos y ya esta firma de este convenio supone una ampliación cualitativa de los que ya venían funcionando y desplegando efectos

y además de la información que se puede intercambiar en el ámbito de la matriculación de niños y niñas

las administraciones hacen consultas y se

en áreas tan diversas como el hecho de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias consultas de epígrafes del impuesto de actividades económicas

en la medida en que las administraciones públicas continúan firmando convenios

facilitando la efectividad del derecho a la ciudadanía no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas

en beneficio de las personas que acudan a la administración educativa a la hora de formalizar

de sus hijos e hijas como decía nosotros entendíamos que la iniciativa no debía centrarse exclusivamente en el procedimiento de matriculación por eso nuestra enmienda hablaba de la administración en general de los procedimiento en su conjunto consideramos

previsión legal que todas las enmiendas que se habían presentado compartían esa misma filosofía por tanto creemos que es una enmienda transaccional que va a ser beneficiosa

agilidad y eficiencia por tanto nos alegramos de que en principio todos los grupos vayamos a votar a favor de ello eskerrik asko

da hitza muchas gracias presidenta no pensaba intervenir pido disculpas porque efectivamente habíamos comentado que iba a ser muy breve pero por alusiones

de discusión en materia educativa he traído un asunto porque es una reclamación de muchísimos padres y madres de nuestra comunidad por supuesto que nosotros tenemos una serie de prioridades en la defensa en materia educativa para nosotros lo principal para ustedes son otras para nosotros lo principal es la defensa de la libertad la libertad de elección de modelo y de centro para todas las familias por supuesto que hay que luchar contra el fraude del padrón todos queremos defender la libertad

y defender también una educación trilingüe y defender una educación sin manipulaciones pero hoy traemos este tema a usted le ha preocupado no firmar con el pp su preocupación ahora es que no firmó usted con el pp está obsesionado con firmar con el pp

nosotros no hemos dejado de defender en ningún momento

nos moleste una firma por eso hoy hemos querido firmar esas declaraciones institucionales porque para que sean declaraciones constitucionales tenían que contar con la firma de todos y por supuesto que en la defensa de esas cuestiones

nosotros estamos y la firma de ustedes desde luego no nos va a sacar del tablero nosotros tenemos que estar y vamos a seguir estando defendiendo aquellas cosas en las que creemos pero por supuesto si tantas ganas tiene usted de firmar con el pp si esa es ahora

haga usted una cosa dedique su tiempo a convencer a los que mandan en su coalición que condenen a eta sí que condenen a eta que reconozcan el daño que causaron a esta sociedad porque por dignidad

no solo con las víctimas no solo con los asesinados hoy recordábamos

el acoso de quienes hoy dirigen su coalición por favor dedique usted su tiempo que hagan ese recorrido democrático que no han hecho por favor que reconozcan el daño causado y su complicidad ya lo han hecho en la audiencia nacional y entonces no tendremos inconveniente en compartir la firma en un papel pero tienen ustedes muchas cosas que hacer y

mucho trabajo que hacer en su propio grupo porque mire yo cuando miro para atrás llevo mucho tiempo en esta cámara cuando miro para atrás sabe de qué me acuerdo de que cuando yo empezaba en política en los años noventa yo era presidente de las nuevas generaciones del pp

y era el líder de jarrai en álava mi ciudad en vitoria hasier arraiz hoy dirige sortu sabe donde estábamos cada uno yo llevaba un lazo azul aquí y

a pocos metros quince metros por delante lo recuerdo perfectamente porque yo desde luego que hablaba con él nunca me negué a hablar con él ni con ninguno de ustedes

de que a diez metros en la plaza de correos de esta ciudad de vitoria en la plaza de correos

termino ya termino ya pero esto son cosas serias como para que usted venga

muchas cosas que hacer sí sí que no me levante la mano porque usted también es alavés usted es parlamentario alavés pues le estoy hablando de lo que pasaba en nuestra ciudad que mi imaginario político partió de ver cómo

hoy estaba en la pancarta diez metros por delante de mí en la plaza de correos lunes tras lunes en esta ciudad dando instrucciones

se le oía desde nuestra pancarta cómo daba instrucciones a los que nos tiraban piedras a los que nos insultaban a los que nos tiraban huevos a los que nos tiraban pintura eso es lo que hacía

después de todo aquello pero no lo olvidamos y ustedes por favor ustedes por favor sepan

y estamos aquí para representar a las personas que con mucha dignidad les plantaron
cara a ustedes durante muchísimos años muchas gracias eskerrik asko